ezberdinekin la

somos la única comunidad autónoma que no tenemos una ley de estas características

y es responsabilidad de aquellos partidos que han tenido responsabilidades de gobierno unos han estado más años otros han estado menos años pero lo que se puede decir es que después de todos esos años en los que han estado el partido nacionalista vasco en el gobierno ahora ha vuelto

y durante los cuatro años que gobernó el partido socialista si bien se aprobó un proyecto de ley municipal pero tras la disolución de las elecciones

asignatura pendiente y allá cada uno también tendrá que asumir

que les corresponda retraso en la ley municipal también sabemos la dificultad de elaborar una ley de estas características por la complejidad

y los niveles institucionales que tenemos pero no por ello deja de ser una ley absolutamente necesaria y más

de una cierta andadura y recorrido de las administraciones públicas y con necesidades concretas a las que hacer frente también es cierto que las posiciones en los partidos

a esta ley quizás eso también dificulta la cuestión a la hora de poder remitir proyectos de ley municipal con el consenso debido

nosotros hemos planteado en nuestra enmienda de transacción un punto

exigiendo al gobierno vasco esa remisión del proyecto de ley municipal consensuada con

diputaciones forales en cuanto a la referencia a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local ya aprobada en las cortes

pues también era una asignatura pendiente y era necesaria esa reforma de nuestro entramado institucional hay que decir que es una ley plenamente constitucional que ha sido avalada por el consejo y por otros informes jurídicos que es una ley absolutamente respetuosa con las competencias las competencias reconocidas en los estatutos

a las comunidades autónomas y las competencias que corresponden a la autonomía municipal además se puede decir que es una de las leyes más consultadas y participadas de la democracia se trata

al principio de estabilidad presupuestaria previsto en la ley de estabilidad presupuestaria la ley orgánica dos barra dos mil doce de hogeita zazpi de abril potencia o su objetivo final

administraciones locales en cuanto a administraciones más cercanas al ciudadano y sobre todo se establecen mecanismos

la prestación de servicios públicos locales y sus sostenibilidad económica que es la mejor garantía de la continuidad de los servicios que prestan las administraciones locales

principalmente a clarificar y simplificar las competencias municipales con el fin de evitar duplicidades entre competencias de las diferentes administraciones públicas

de una administración una competencia para buscar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y en la prestación de los

involucradas establece también los mecanismos para que desde la estructura organizativa se dé respuesta

de acuerdo a los principios de eficiencia equilibrio financiero eficacia transparencia y también se determinan los mecanismos para garantizar

riguroso como decía anteriormente esta ley se ha elaborado en el marco de las competencias básicas del estado pero con un respeto a las competencias de las comunidades autónomas

por el gobierno para apoyar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales y sobre todo evitar situaciones

y se encuadra dentro del contexto de medidas de las reformas estructurales incluidas

de españa por lo tanto se va a garantizar la suficiencia financiera

que tienen las administraciones municipales creo que es también oportuno hacer una reflexión porque en un momento de crisis económica del que ya afortunadamente estamos empezando a salir

de las administraciones públicas cuando ha habido que adecuar también y cumplir objetivos de déficit determinados

instituciones cuando se ha visto que el gobierno de mariano rajoy

ha tenido que aprobar planes de pago a proveedores para que administraciones públicas como ayuntamientos y comunidades

deudas que tenían y como decía la crisis económica ha puesto muchas cuestiones de manifiesto los déficit del sistema en este caso de las administraciones públicas y la necesidad

reformas específicas y una reforma del entramado de la administración pública en su integridad y por otra parte hay que adaptar

y en estos momentos y como todos sabemos

atrás en definitiva creemos que tanto los objetivos de esta ley como los objetivos

al parlamento vasco de ley municipal y que esperemos que sea a la mayor brevedad posible se mejoren los servicios que se prestan a los ciudadanos que se haga más con menos

la sostenibilidad y la transparencia y por lo tanto como vemos que sigue siendo una asignatura pendiente

el ejecutivo del partido nacionalista vasco buscando el debido consenso con el resto de instituciones nos remita este proyecto

gracias presidenta nuestra enmienda de totalidad consta básicamente de tres puntos en el primero de los puntos queremos mostrar nuevamente nuestro rechazo a la ley nacional de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobada por el gobierno de españa que no es que sea

mala de solemnidad es nefasta y una nueva oportunidad perdida es un nuevo disparate del gobierno actual que demuestra en fin el déficit que sufrimos en cuanto a quien nos gobierna desde el gobierno de españa

sino que es mala mala de solemnidad señora garrido por eso

proponemos que este parlamento apoye el recurso de inconstitucionalidad que varios grupos parlamentarios del congreso de los diputados recientemente acaban

en relación a esta ley ya hemos debatido no se trata de duplicar debates nosotros presentamos nuestra correspondiente enmienda de totalidad

nuestro recurso de inconstitucionalidad en esta enmienda de totalidad que nosotros presentamos y en este recurso también de inconstitucionalidad se recogen resumidamente cuáles son las razones por las cuales no compartimos esta ley

la estructura municipal en el conjunto de españa se mantiene la infinidad de municipios la mayoría muy reducidos que siguen manteniendo

una existencia casi fantasmal y sin capacidad de prestar los mejores servicios públicos de los ciudadanos se refuerza a las diputaciones provinciales y digo en este caso las diputaciones provinciales cuando resulta que son órganos infrademocráticos se quitan determinadas competencias a los municipios y se otorgan determinadas competencias a las diputaciones provinciales

órganos ni siquiera plenamente democráticos se plantea una muy mala nefasta regulación de las competencias no se lleva a cabo la necesaria

desmesurada no se avanza en la profesionalización de la administración local que no es la privatización de los servicios ni mucho menos

no se avanza en la profesionalización de la administración local no se mejoran ni se plantean mejoras en los controles internos y externos de las administraciones

todo ello y algunas cosas más hace que tengamos una

absolutamente nefasta el objetivo debería ser ampliar la democracia no recortarla que es lo que el gobierno de españa plantea y planteó con esta modificación legal propone un abaratamiento de la democracia nosotros somos más partidarios de ensanchar la democracia por lo tanto en este primer punto lo que planteamos es nuevamente que nos posicionemos

de esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local evidentemente es necesaria una ley de administración local pero no esta

otro tipo de modificaciones legales empezando con la propia modificación de la constitución española que clarificara las competencias el gobierno de españa las diferentes comunidades autónomas y los ayuntamientos suprimiendo de paso las diputaciones y llevando a cabo un proceso de fusión de municipios en el segundo punto proponemos que nos reafirmemos en la importancia de la autonomía local y la trascendencia de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades la democracia la prestación de servicios públicos descentralizados y la cohesión social

a la labor que vienen realizando lo cual en absoluto choca con nuestra pretensión de llevar a cabo una fusión de municipios

de que tengan la suficiente entidad y el suficiente volumen para que puedan prestar realmente servicios públicos esenciales al conjunto

en el tercer punto lo que proponemos es instar al gobierno vasco a remitir a la cámara un proyecto de ley municipal de euskadi durante el primer semestre del presente año dos mil catorce

y ahí evidentemente marcamos algunos de los objetivos que nosotros consideramos que son esenciales por un lado reformar y modernizar la estructura de nuestra administración local clarificar y concretar las competencias municipales garantizar la financiación suficiente para que los municipios puedan ejercitarlas óptimamente y permitir la participación de estos en el consejo vasco de finanzas cosa que

la reforma de la propia ley de territorios históricos por lo tanto apoyo a los ayuntamientos apoyo a las competencias municipales se trata de una

competencias claras y capacidad y financiación suficiente para poder ejercer esas competencias de la manera que lo exigen los ciudadanos se ha dicho por activa y por pasiva que somos la única comunidad autónoma sin ley municipal

distintas responsabilidades a distintos gobiernos yo creo que aquí los responsables son muchos distintos gobiernos vascos distintos partidos políticos distintas diputaciones y el propio entramado institucional

todas estas dificultades por nosotros no

sí también quiero decir que es importante tener una ley municipal pero es importante tener sobre todo la mejor ley municipal posible en fin llevamos ya muchísimo retraso

cuanto antes ya digo con el objetivo de clarificar las competencias que deben prestar los ayuntamientos y garantizarles suficiencia financiera para

será cuestión de que cada uno de los grupos planteen sus enmiendas y a partir de ahí podamos tener la mejor ley municipal posible no sé si veo yo al gobierno con excesivo interés de traer cuanto antes esta ley municipal

precisamente en el año dos mil diez cuando ya se acercaban las elecciones municipales y forales y nos decíamos unos a otros que había que traer esta ley cuanto antes y antes de que se produjeran esas elecciones porque después iba a ser muy complicado poder aprobarla en fin veremos a ver qué es lo que ocurre

trae esta ley municipal cuanto antes nosotros lo que pedimos es que esta ley se traiga antes del treinta de junio tal y como señala el calendario legislativo nosotros votaríamos a favor de nuestra enmienda y nosotros también estaríamos dispuestos a votar a favor del segundo de los puntos de la enmienda socialista

a una enmienda que se aprobó en este parlamento el pasado once de abril del dos mil trece que nosotros no apoyamos

se instaba al gobierno de españa a reflejar en esa ley de administración local la

y nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento por eso no podríamos votar a favor del primero de los puntos de la enmienda socialista el punto número dos sí podríamos votarlo en todo caso

gracias presidenta los socialistas todavía albergábamos la esperanza de que quienes

cumplieran lo que este parlamento decidió por amplia mayoría con su voto señores del pnv hace ya un año y que han incumplido de manera flagrante

cuando rechazó la ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y cuando instó al gobierno vasco

en la cámara un proyecto de ley municipal para este mismo semestre a la vista de la enmienda a la totalidad que el pnv ha presentado en la moción que hoy es objeto de debate parece claro que esa esperanza era un tanto ingenua nos reafirmamos y creame que lo sentimos en las críticas a este incumplimiento que nos parece muy grave hoy es el día en que la ley de reforma local del gobierno de rajoy lejos de ser rechazada por ustedes como se aprobó en este parlamento ha sido legitimada por el partido que sostiene al gobierno del lehendakari urkullu y hoy es también el día que la ley municipal

no se sabe absolutamente nada cuando ya debiera estar prácticamente ultimada para ser remitida a este parlamento y hoy es también el día en que el partido

se desdice con su enmienda de todo lo que aprobó

y también de lo que acordó con nosotros el pasado septiembre en fin

este gobierno y el partido que lo sustenta han incumplido una resolución que los socialistas hicimos vales cuando el pasado mes de septiembre firmamos con ustedes

y más adelante el veinticuatro de octubre en su comparecencia ante el pleno de esta cámara el lehendakari con toda solemnidad daba cuenta de las previsiones del calendario legislativo y entre ellas fijaba la ley municipal cuya aprobación y remisión la fijó para el mes de junio del presente año de manera que además de un mandato parlamentario

y digo teníamos porque nos tememos que no hay ningún indicio racional de que se vaya a cumplir lo que el lehendakari prometió porque inmediatamente después del lehendakari llegó el tío paco con la rebaja y el portavoz del gobierno el señor

de anticipar lo que hoy confirma el pnv al adelantar a un medio de comunicación que quizás el proyecto de ley no se remita en la fecha prevista sino a lo mejor en septiembre

que dicho sea de paso el señor erkoreka tampoco se molestó

por el trabajo desarrollado por el ejecutivo para aprobar el proyecto de ley de acuerdo con el mandato parlamentario quizás

se limitó a comunicarnos que se habían mantenido reuniones con dos de las tres diputaciones y también con eudel pero fue incapaz de responder cuál había sido el resultado de esas gestiones ni qué perspectivas se habían abierto para poder contar con una ley en el plazo previsto

nos dijo simplemente lo que ya nos dijo un año antes cuando su gobierno rechazó nuestra proposición de ley municipal que si se hubiera aprobado hubiéramos ganado muchísimo tiempo

a lo que decidiera el gobierno de rajoy para que pudiéramos aprobar en uso de nuestras competencias el marco legal de nuestros ayuntamientos esa fue la respuesta del gobierno

con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que entró en vigor el pasado treinta y uno de diciembre no sería adecuado dijo el portavoz del gobierno presentar un borrador de anteproyecto desconociendo los efectos

del régimen local de euskadi y eso nos lo decía el pasado once de diciembre cuando la ley ya había sido aprobada en el congreso de los diputados con los votos de su partido

con los votos de su partido también en el senado y sin embargo el señor erkoreka aún no sabía fíjese usted que curioso

una ley que ustedes señores del pnv habían aprobado en el congreso y en el senado

que según vendieron a la opinión pública iba a salvaguardar nuestras propias competencias en materia municipal porque el pnv había conseguido blindar nuestro régimen foral algo que parece que ahora no está ya tan claro ni siquiera para ustedes porque mucho nos tememos que con el señuelo de la foralidad lo que el pnv ha acabado pactando no ha sido otra cosa

diputaciones forales en una especie de delegados del gobierno central para lo que afecte a los ayuntamientos lo que ha hecho el pnv no ha sido otra cosa

y que también defendimos en madrid y eso no evitó que además presentásemos un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ustedes aprobaron vuelvo a repetir en el congreso

sirve para arrebatar competencias y capacidades de actuación especialmente a los pequeños ayuntamientos y desmantelar servicios públicos

al empleo público y esto afecta señores del pnv también a los ayuntamientos vascos porque lo que se ha dicho desde eudel en fechas por cierto bastantes recientes no invita precisamente al optimismo lo que ha dicho tanto la presidenta de eudel ibone bengoetxea como su vicepresidente jose antonio santano es que la ley de reforma local

es una ley preocupante para la autonomía municipal y para los servicios públicos que afectan a los ciudadanos y lo dicen al mismo tiempo una representante nacionalista y un representante socialista en esa asociación y también nos dicen que nos preocupa

teniendo tres sistemas locales diferentes uno por cada territorio justo por cierto lo contrario de lo que el consejero erkoreka celebraba hace no mucho tiempo

aplicada aquí en virtud del pacto con ustedes de manera más atenuada podremos operar con un criterio más laxo que lo determinará cada diputación en cada territorio en función de la realidad financiera de los municipios olvidándose también de lo que dicen catorce ayuntamientos vascos que se han sumado al recurso presentado en toda españa por más

y que entró el pasado veintiocho de marzo en el tribunal constitucional

lo dirá el tribunal constitucional y no usted ni el partido popular y en cualquier caso

habrá que recordarles a ustedes que son precisamente las corporaciones locales quienes mejor han cumplido con los objetivos de déficit a excepción de dos ayuntamientos madrid

curiosamente en manos del partido popular catorce ayuntamientos decía del país vasco de diferentes colores políticos y que representan aproximadamente un tercio

las pobres explicaciones que hasta ahora hemos recibido del gobierno vasco nos suenan más y siento decirlo pero es así a excusas para tapar su inacción que a otra cosa o lo que sería peor a falta de voluntad para que la ley municipal

o tal vez una mezcla de varias cosas porque no es ya que el gobierno ande retrasado que va o que aún no tenga un texto o un borrador preparado es que ni siquiera tenemos conocimiento ni siquiera de cuáles van a ser las líneas generales de la ley que están preparando sabemos únicamente que el gobierno se reúne tarde con diputaciones y con eudel y que de esa reunión surge tarde también un grupo de trabajo para buscar consensos entorno a la ley y que previamente diputaciones ayuntamientos y gobierno

de la ley española que al parecer el pnv y su gobierno desconocen a pesar de haber respaldado esa ley en ambas cámaras y a qué suena todo esto pues suena a tácticas dilatorias ya conocidas para que la ley nunca se lleve a puerto y conocemos de sobra esa estrategia porque el pnv la ha venido aplicando

o desde la oposición haciendo imposible por ejemplo que la ley municipal del anterior gobierno se aprobase recurriendo a través de las diputaciones a la comisión arbitral por supuestas invasiones de competencias acusación que por cierto se demostró

infundada y con posterioridad desde el gobierno se hizo imposible también que la ley se pudiera retomar a través de la proposición que los socialistas presentamos en enero del pasado año por lo tanto entienda usted que tengamos muchas razones para desconfiar y también para exigirles que cumplan los acuerdos parlamentarios y lo que esta cámara decide y le aviso que no vamos a tolerar ni nuevas maniobras ni nuevos aplazamientos de una ley que los ciudadanos necesitan y que es básica para nuestro entramado institucional

en el primer semestre de este año porque damos por perdido el primer semestre pero sí les exigimos que esa ley se pueda debatir antes de finalizar el presente año
en esta cámara eskerrik asko pastor jauna

recordarán también ustedes como el treinta de mayo en esta cámara aprobamos una proposición de ley en la que instábamos al gobierno a realizar las gestiones que sean necesarias

refleje expresamente nuestra singularidad y en este sentido el gobierno ha trabajado en paralelo los dos ámbitos diferenciados por una parte se ha procurado el mantenimiento del actual sistema de régimen local en euskadi y el reconocimiento de un marco

del estatal y es así reconocidas estas peculiaridades el gobierno trabaja en el diseño de dicho marco propio y su desarrollo a través de la ley municipal y lo quiere hacer con el mayor consenso posible

en el que participen todos los niveles institucionales y en el que estén representadas

todas las sensibilidades políticas cuáles son esas vamos a repasar ya lo ha hecho el señor

las mayores novedades que presenta esta ley la ley de racionalización respecto a las competencias municipales

las competencias de los ayuntamientos pero nosotros los ayuntamientos vascos no vamos a sufrir esa restricción y lo conoce porque así lo está dispuesto en la disposición adicional

a las instituciones vascas competentes la facultad de incrementar las competencias a los municipios a través de su legislación sectorial por tanto conclusión

serán las que esta cámara y las que los órganos forales determinen

ese corsé estatal alguno que impida al legislador sectorial vasco la atribución a los municipios de las competencias que nosotros consideremos

de los municipios entendidos como auténticos gobiernos locales y no como mero prestadores de servicio y en esto

defendiendo y apuntalando el principio de autonomía local algún otro aspecto que ha sido señalado también

efectivo ya se lo dijo el señor erkoreka el consejero corresponderá a las diputaciones forales el desarrollo de los criterios para determinar el coste efectivo y yo tengo bastante claro supongo que ustedes también de desarrollar esos criterios las diputaciones deberán tener en cuenta criterios de estándares de calidad y no únicamente criterios economicistas

madrilek esaten duen moduan ala otro tema que también preocupa a los ayuntamientos se va a producir la privatización de los servicios en los municipios inferiores a veinte mil habitantes

esta es una cuestión que queda en manos de las diputaciones forales y que en todo caso

sí que ha anunciado que no procederá a realizar esta coordinación la diputación foral de gipuzkoa parece que por boca de la señora errekondo

si así lo solicitan los ayuntamientos entonces maeztu jauna pribatizaziorako

por no tener en cuenta el nuevo panorama dibujado por la ley básica estatal

una ley municipal sin tener en cuenta todas estas cuestiones si el gobierno hubiera cerrado los ojos hubiera mirado para otro lado y no hubiera tenido en cuenta la ley estatal seguro que hubiera traído el gobierno la ley aquí para abril la ley municipal para abril seguro pero eso hubiera sido una irresponsabilidad mayúscula

el alubión de críticas y el rosario de iniciativas a que ello hubiera dado lugar

la señora garrido a la hora de defender lo indefendible es decir de defender la ley de racionalización de las entidades locales

no no es simplificar es quitárselas como ha dicho la señora otadui en este caso mutilar las competencias

se las quita y se las da directamente a las diputaciones en algunos casos y en otros casos le da esa posibilidad de que se puedan quitar es decir a la institución más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas se le quita esas competencias

zarete mesedez eskerrik asko con la posibilidad de que además

directamente o indirectamente que ya sabemos lo que eso supone en muchos casos han convertido ustedes con esta ley el principio

a la hora de prestar los servicios públicos en la descentralización

totalmente economicistas lo que están ustedes haciendo

mercantilizar los servicios públicos y que diga alguien en esta cámara que se está empezando a salir de la crisis hay que tener un poquito más de cuidado un poquito más de cuidado cuando en españa hay una tasa del paro del veinticinco seis por ciento solo superada en europa

una tasa del paro del diecisiete coma cinco por ciento solo superada por grecia españa y croacia

por chipre decir que se está saliendo de la crisis

con cada vez más personas en riesgo de exclusión social cuando no en pobreza es cuanto menos una irresponsabilidad decirlo eta

sí gracias señora presidenta yo creo que

la situación que desearían sería otra que hubiéramos sido rescatados que la prima de riesgo estuviera en los valores en los que estaba hace año año y pico lo que pasa es que el gobierno del partido popular

muchas asignaturas pendientes asignaturas pendientes también que tiene el partido nacionalista vasco y el gobierno del partido nacionalista vasco cuando vemos según las últimas cifras y los datos que estamos conociendo por ejemplo que el paro está creciendo más en la comunidad

es esa la tarea en la que se tiene que empeñar el ejecutivo del partido nacionalista vasco

seguir en el catastrofismo pero es que afortunadamente

hay un gobierno del signo que sea pero en este caso es el del partido popular que está haciendo las cosas bien porque además así lo están reconociendo los organismos internacionales y

y también nos va bien a los vascos o nos debería de ir bien siempre obviamente a que aquí

tenemos muchas asignaturas pendientes y muchas cuestiones que con urgencia tiene que abordar el partido nacionalista vasco como es la competitividad de nuestras empresas y como es el tema del desempleo la cifra también a la que usted hacía referencia señor

en cuanto a algunas de las cuestiones que se ha hecho referencia

de que es un disparate pero señor maneiro ya sé que usted tiene que intervenir mucho en este parlamento tiene que simplificar pero hay cuestiones en las que no se puede simplificar no se puede salir

una ley de disparate y no hace referencia a ninguno de los aspectos de esa ley

en qué aspectos concretos de esa ley le parece que es un disparate dígame qué disparate le puede parecer que una ley clarifique competencias de que una administración se haga cargo de una competencia creo que esto es una expresión que además utiliza usted en este parlamento de forma reiterada

mecanismos de cómo se pueden prestar los servicios de forma más eficiente a os ciudadanos de que haya un control

dígame si eso son disparates o barbaridades y en cuanto

en vigor y esta ley ha tenido un amplio consenso ha sido además ampliamente informada con informes favorables al final ha tenido el voto favorable también de otros partidos políticos del partido nacionalista vasco aunque luego salga la señora

respecto a la autonomía municipal le parece que quedan mutiladas pero ahí está el voto favorable del partido nacionalista vasco y ahí están cuestiones de esa ley tener que ser aplicadas en euskadi obviamente desde el respeto riguroso a nuestro entramado institucional porque además así también lo ha creído el gobierno

nacionalista vasco disposiciones que hacen referencia a nuestra singularidad

tal y como además marca la constitución pero decía que me voy a hacer referencia a algunos aspectos de la ley y muy rápidamente porque no sé cómo les puede parecer mal que se hable de modernizar optimizar y potenciar aquello que es necesario para que se pueda consolidad la sociedad del bienestar no sé

que redimensione el sector público local para que se

mecanismos de estabilidad presupuestaria sí es que con el partido socialista y pactamos una reforma de la constitución precisamente para que las administraciones publicas se ajusten al principio de estabilidad presupuestaria sostenibilidad financiera pago a proveedores

por qué se dice cuando es un proyecto que desarrolla un marco competencial que ejerce la autonomía local desde la responsabilidad constitucionalmente protegida se contempla la autonomía local apelando al principio de lealtad institucional entre instituciones

un modelo territorial que respeta la autonomía municipal y que precisamente actúa como palanca para dar una mejor cobertura a los servicios a los ciudadanos no sé por qué hablan de privatización cuando en ningún artículo de la reforma aparece la palabra privatización y les insto a que me digan un solo artículo de la ley en donde aparece la palabra

cuando además se hace referencia al artículo nueve del estatuto básico del empleado público

y de las administraciones públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos en los términos que en la ley de desarrollo de cada administración pública se establezca no sé cuando hablan de pérdida de miles de empleados públicos a qué artículo de la ley se han ido porque los

y el ejercicio de sus funciones y la reforma precisamente lo que hace es proponer un modelo

a la dirección política y el funcionario a la gestión técnica que es lo que tiene que ser en una administración pública para que funcione de forma eficiente de forma transparente que los servicios se presten con calidad que es lo que están demandando los ciudadanos

quería hacer referencia a estas cuestiones a una más con el permiso

cuando se garantiza una doble cobertura territorial en la prestación de los servicios y solo cuando se incumpla el objetivo de la estabilidad presupuestaria el objetivo de deuda o de regla de gasto se habilita una respuesta de la diputación de conformidad con los municipios afectados siempre de conformidad

yo creo que lo que tiene que hacer este ejecutivo es remitir a la mayor brevedad posible el proyecto de ley municipal buscar el consenso debido que ustedes más de dos décadas

de ley municipal eskerrik asko mistoa upyd

sí gracias presidenta no sé si merece la pena insistir ante determinados parlamentarios que no quieren escuchar y que mientras

la señora garrido no haya escuchado los argumentos que yo he planteado para posicionarnos en contra de la ley de sostenibilidad

porque dado unos cuantos he dicho que es una oportunidad perdida he dicho que es una ley que está dedicada expresamente a otorgar más poder a las diputaciones provinciales que no actualiza la estructura municipal que mantiene miles de ayuntamientos minúsculos que distribuye mal las competencias que efectivamente como aquí se ha dicho

que privatiza servicios y que no moderniza nuestra administración que quita la competencia de servicios sociales a los ayuntamientos mientras mantiene la competencia de urbanismo en fin todo esto y alguna cosa más es lo que nos llevó a nosotros a presentar

y algunas otras a presentar un recurso de inconstitucionalidad que yo se le voy a entregar para que lea tanto la enmienda de totalidad de upyd como el recurso

ha planteado básicamente con esta ley no es modernizar la estructura del estado no es modernizar la administración local no es prestar mejores servicios públicos lo que ha intentado ha sido básicamente abaratar la democracia que es su gran abaratar la democracia y mantener sus ámbitos de poder cosa que es ciertamente importante para el partido popular esto es lo que básicamente ha hecho por lo tanto todo esto es lo negativo de esa ley lo que hace y lo que no hace que no respete la foralidad o invada competencias sobre todo es

y todo aquello que plantea que se haga esto es lo negativo y efectivamente se hablaba aquí lo decía la portavoz del grupo nacionalistas vascos que quiere que los ayuntamientos sean auténticos gobiernos locales correcto pero es que para eso es indispensable llevar a cabo una fusión de municipios porque

reducida estructura de los ayuntamientos les impide realmente aprovechar

óptimos servicios públicos la única forma de que puedan ser auténticos gobiernos locales con competencias claras y tengan una financiación suficiente es que tengan el volumen suficiente para poder ejercer esas competencias ya digo como se ha hecho en otros países

yo solicito el voto para nuestra enmienda plantea tres asuntos básicos y fundamentales que una mayoría de grupos podríamos compartir rechazo de la ley nacional aprobada por el partido popular reafirmar la importancia

y pedir al gobierno que cumpla en definitiva su calendario legislativo y que traiga la ley municipal antes del treinta de junio y que esta pueda cumplir los objetivos que nosotros planteamos en esta enmienda reformar y modernizar la estructura de nuestra administración clarificar y concretar las competencias municipales garantizar la financiación suficiente para que los municipios puedan ejercitarlas óptimamente y permitir la participación de estos

vasco de finanzas es decir la mejor ley municipal posible la ley que más les guste a los alcaldes del pnv no la ley que más interese al conjunto de los ciudadanos esto es lo que nosotros queremos

para terminar yo exijo que la ley se debata aquí

aquí que se consensue aquí y que se apruebe aquí ustedes pasan más tiempo hablando de lo que hace el gobierno de españa que de lo que hacemos aquí de lo que podríamos hacer aquí

se pasan ustedes el tiempo hablando de lo que les gusta o no les gusta a las diputaciones forales o a eudel o a los ayuntamientos o a los alcaldes del partido nacionalista vasco

de diálogo y de acuerdo es aquí donde están representados los ciudadanos vascos por lo tanto traigan la ley cuanto antes no pongan excusas tráiganla aquí y aquí negociaremos y aquí acordaremos y aquí aprobaremos la ley

aparece la palabra privatización pero aparece muchas veces la palabra modernización

de hospitales públicos cuando hablaba de modernización de la educación era restricción del presupuesto a la educación pública y aumento de los colegios concertados cuando hablaba de la mejora y la eficiencia en el servicio de agua potable al final se acababa transformando en un proceso de venta del canal de isabel segundo por lo tanto permíteme usted que por lo menos tengamos un cierto miedo

en lo mismo en recortes y en privatización señora otadui nosotros también queremos lo mejor

y además la queremos básicamente acordada con todo lo que se pueda acordar

en el que podían haber estado empezando ustedes a tejer esos acuerdos y esas complicidades

dos reuniones hace cuatro días como quien dice y hasta entonces qué han hecho

si tenía un compromiso avalado por ustedes por cierto de empezar a tejer complicidades de empezar a trabajar consensos de traer un proyecto de ley que podíamos tener aprobado por cierto

que había venido a este parlamento por parte de un gobierno socialista porque me reconocerá usted

al hilo de lo que vaya ocurriendo en cualquier caso entiendo que los compromisos cuando uno los adopta

son para cumplirlos no para después empezar a marcha en otra estrategia distinta

no nueve meses más tarde se empiezan a hacer primeras reuniones para ver lo que da de sí este supuesto consenso

si nos atenemos al discurso del portavoz del gobierno de que no se podía aprobar

de la ley espero que ahora no nos venga el señor erkoreka diciéndonos que como

igual hay que esperar a ver lo que dice el tribunal constitucional no sea

a tejer esos consensos que como el velo de penélope ustedes se dedican a tejer y destejer

de seriedad además no saben ni ustedes cuál es el efecto de esa tutela foral

por eso dicen que no conocen los efectos de la ley por eso el portavoz de su partido en el ayuntamiento de vitoria dice que está muy preocupado por los efectos que va a tener la aplicación de esa ley en el ayuntamiento de vitoria por eso la señora uxue barkos la marca blanca de ustedes en navarra

para los ayuntamientos por eso la presidenta de eudel de su partido dice que corremos el riesgo de tener tres modelos municipales distintos en función del criterio discrecional

que puede haber dicho hoy el señor bilbao que no va a hacer no sé qué y mañana se e puede cambiar el chip y decir que sí lo hace porque no está regulado por ley

de la administración central para hacer cumplir una normativa básica porque en su inmensa mayoría a pesar de la salvaguarda foral

es de carácter básico y por lo tanto ustedes lo que van a hacer es aplicar normativa básica pero a través de las diputaciones forales y en un caso lo podrán hacer bien y en otros no y en un ayuntamiento y en una diputación se hará de una manera y en otros de otra

eso es jugar otra vez a los tres países y a los tres territorios
eso no es hacer país eskerrik asko pastor jauna

que van a ganar la votación no sé cuál de las enmiendas saldrá adelante conseguirán su objetivo darle un tirón de orejas al gobierno pero ante un incumplimiento que a día de hoy insisto no existe perfecto tendrán su titular

nuestro objetivo es bien distinto nosotros queremos la mejor ley municipal para euskadi y queremos que nazca desde el consenso por favor ustedes también céntrese en este objetivo y céntrese en atender a las necesidades de todos

hoy los socialistas vascos queremos hablar en esta cámara de san sebastián no de la capitalidad de la cultura dos mil dieciséis que parece ser el único tema de la ciudad que preocupa a algunos

la proposición no de ley que defiendo hoy aquí no puedo decir que sea de cosecha propia

en el ayuntamiento de san sebastián con esta iniciativa intentamos realizar una visión global

además de trasladar un acuerdo alcanzado entre las distintas formaciones políticas componentes del ayuntamiento de san sebastián

la ciudadanía donostiarra se ha encontrado con hechos y declaraciones cuanto menos confusas con respecto a propuestas

para la ciudad de donostia san sebastián respecto a las cuestiones ferroviarias de su competencia

consideraron oportuno alcanzar un posicionamiento claro y sensato por parte de las demandas municipales así como lograr también un compromiso igual de claro por parte de esta cámara vasca hace un año

y prioridades de su gestión para los próximos cuatro años en dicha intervención dijo debemos priorizar nuestras obras y en el actual escenario presupuestario es absolutamente imposible continuar en este momento con lugaritz la concha y la concha morlans

de esta forma la consejera desechaba el proyecto de metro donostialdea a pesar de que las obras de la pasante ferroviaria ya estaban adjudicadas por cierto que todavía no sabemos cuánto nos va a costar a los vascos esta paralización de las obras

la señora consejera expresó la apuesta clara de su departamento por la mejora de la red ferroviaria de cercanías

y por la parte conocida como topo como si la apuesta por una cosa fuera incompatible con la otra

gestionadas por eusko trenbideak para de esta forma mejorar las conexiones

con las localidades englobadas en el ámbito metropolitano como rentería

así se recoge hace un año la declaración institucional y ser recoge hoy también en la proposición

pero creo que todos sabemos sé que somos conscientes que mientras no se haga realmente la pasante ferroviaria en san sebastián va a ser imposible mejorar realmente esta red ferroviaria pues bien lo que en su día el gobierno vasco consideraba imposible de construir ahora vemos que es algo viable

ahora parece ser que la propuesta del anterior gobierno vasco se pone en valor y el departamento de medioambiente y política territorial ha decidido retomar la construcción de la pasante ferroviaria de san sebastián

pese al tiempo perdido con la decisión del actual ejecutivo de paralizar el proyecto anterior para los socialistas vascos y en concreto para los socialistas donostiarras

el que vaya a mejorarse el servicio de euskotren uniendo las dos líneas actuales y aprovechando esta situación para crear nuevas paradas en la ciudad a modo de metro se apuesta por una pasante por el centro de la ciudad con una conexión con la universidad algo que para los socialistas es imprescindible porque debemos de lograr acercar la universidad a todos los alumnos y alumnas guipuzcoanos independientemente de dónde residan contará tambien que una parada en la concha que incluya salida peatonal por

y el soterramiento de la estación de la plaza easo un proyecto

ambos proyectos son almas gemelas y si no son gemelos

el gobierno vasco contará con el apoyo de los socialistas para el desarrollo de la pasante ferroviaria

considerar que hay otras prioridades ferroviarias en san sebastián y gipuzkoa

por el centro de donosti prioridades como por ejemplo la estación de loiola o el tramo a galtzaraborda de euskotren para los socialistas como ya he dicho anteriormente una iniciativa no es incompatible con la defensa del resto y muestra es que en esta proposición no de ley los socialistas pretendemos que el parlamento vasco inste al departamento de medioambiente y política territorial del gobierno vasco a que incorpore entre las obras a desarrollar por parte de euskal trenbide sarea el viaducto

la nueva infraestructura está íntimamente vinculada a la transformación

con la nueva estación se renovará y regenerará un espacio urbano actualmente residual y convertir la infraestructura ferroviaria que en la actual es una barrera

puedan llegar a un sentirse cómodos e incluso pueda ser un referente arquitectónico

hoy absolutamente condicionada por el paso del tren de tal forma que la futura infraestructura ferroviaria permita regenerar urbanísticamente todo el área y dé vida comercial y peatonal a un ámbito donde solo hay un talud

y que constituye un freno para movilidad del barrio

en un nuevo espacio público de calidad con aceras zonas ajardinadas y de estancia paseos y bidegorris pero no solo eso consideramos más

sino que creemos necesario que el gobierno vasco debe disponer de crédito necesario para que la conexión del metro

así como a continuar con la elaboración del proyecto de ejecución dotando para ello las partidas presupuestarias necesarias en los próximos ejercicios para garantizar

pero tenemos que ser más ambiciosos aún ya que gracias al intercambiador contemplado en riberas de loyola se enlazará con la red de cercanías de renfe

al ochenta por ciento de los guipuzcoanos y guipuzcoanas por eso hoy también

al gobierno vasco y al ministerio de fomento a través de adif a iniciar entre ambas instituciones los contactos necesarios con el objeto de estudiar

y que formalicen de una vez por todas el convenio correspondiente para su construcción

que nos piden los donostiarras y es lo que bildu el partido socialista el partido popular y el partido nacionalista vasco acordaron por unanimidad en el ayuntamiento de donosti san sebastián por eso esperamos que hoy podamos dar ejemplo de consenso y aprobemos esta enmienda transaccional

acordada con el partido socialista el partido popular y el partido nacionalista vasco esperemos que bildu y upyd puedan dar su voto favorable también

muy brevemente porque hay un acuerdo y eso al menos en el caso de quien les habla

y también muy brevemente porque estos aspectos ya han sido debatidos en numerosas ocasiones no solo

razonable para debatir estos temas sino también en esta propia casa en este parlamento no en comisión que también sino incluso en este pleno

del especial interés que hemos demostrado unos y otros en relación con san sebastián dos mil dieciséis y sus peculiares o tristes circunstancias diciéndole que lamentablemente los problemas

no se nos escapan son tantos que no podemos dejar de identificar ninguno de ellos este es uno de ellos también pero desde luego

la triste situación por la que atraviesa san sebastián en relación con la incapaz gestión que se está desarrollando en torno

tan interesante para san sebastián y para el conjunto de euskadi como es la capital cultural debe de tenernos y debe ocupar mucho de nuestro tiempo

antes a una enmienda de transacción de un acuerdo y es una enmienda que entre otras cosas

que el estudio y el diseño de los proyectos de movilidad que se vayan a hacer

se tenga en cuenta a todas las instituciones y sean coordinados los proyectos entre todas las instituciones esto que parece de sentido común no siempre se produce en euskadi es cierto y por eso no está mal que lo remarquemos pero

señorías qué es lo que hace falta para mejorar la eficiencia y las frecuencias en este caso

metro o cualquier infraestructura de estas características del mundo desarrollado

que faltan y las mejoras en la red ferroviaria preexistente el objetivo

en un área metropolitana vertebrada a través de esta infraestructura y con un buen sistema de transporte y esto efectivamente es lo que ofrece un metro

con un aumento de frecuencias que conecte por cierto como usted también bien ha dicho de una manera rápida ágil y eficaz las localidades que van desde zarautz

con la famosa pasante donostiarra lo hemos dicho también en numerosas ocasiones

no es un proyecto para san sebastián que también es un proyecto para el conjunto de gipuzkoa fundamentalmente es una proyecto para el conjunto de gipuzkoa

probablemente uno de los ejemplos sobre los que menos se puede sacar pecho no por el proyecto en sí que se pretende desarrollar

más que razonable sino porque el anterior gobierno dejó ese proyecto empantanado la ejecución de las obras mejor dicho

no han sido finalizadas entre otras cosas si nuestra información no es errónea por falta de recursos económicos motivo por el cual el gobierno actual también muestra las dificultades para reiniciar las obras del barrio de loiola que como ustedes saben los que son de san sebastián y conocen la zona son unas vías que dividen el barrio de loiola a través de un muro en dos y ese es uno de los objetivos a solucionar pero nos debería hacer reflexionar también

sin tener garantizada su financiación porque además de por muchas cosas

en este caso de los usuarios no es solo que denoten una gestión mejorable una previsión mejorable en la ejecución de las obras sino que también frustramos

algo a ponderar y a tener siempre en cuenta las expectativas generadas pero además

el anterior viceconsejero decía que había proyecto dice que hay proyecto actual le hemos oído decir que no existe un proyecto esto también deberíamos de ser capaces

que existan estas discrepancias entre gobiernos aunque sean de diverso color y sucesivos claro el grupo parlamentario

ya propuso una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma del dos mil catorce precisamente para la ejecución de esta infraestructura y en aquella ocasión cuando se trataba de consignar

no fue respaldada esa enmienda y hoy se respalda a través de esta enmienda de transacción en cualquier caso señorías y voy terminando que aprobemos proposiciones no de ley que lleguemos a acuerdo en torno a estas

en torno a lo que hay que hacer o no hay que hacer que instemos al gobierno a hacer no sé qué cosas está muy bien

es la financiación porque estas proposiciones no de ley estas voluntades manifiestas e inequívocas de los grupos parlamentarios

si no hay consignación presupuestaria si no se materializa esa apuesta por parte del gobierno o de los grupos que sustentan al gobierno en este caso el grupo que sustenta al gobierno a la hora de impulsarlas y materializarlas con la consiguiente consignación presupuestaria

de que este tipo de acuerdos una vez más caiga en saco roto

de una atención especial por parte del gobierno vasco en materia de infraestructuras

un país vertebrado y equilibrado es una obviedad

va uno o dos o tres pasos por detrás de los otros dos territorios históricos y fundamentalmente por su configuración y por

varios pasos por detrás de bizkaia y de bilbao y esto es algo que podremos coincidir todos

por eso insisto que está muy bien que acordemos pero es que yo recuerdo muchos acuerdos

habidos en el pasado y hoy estamos como estamos y gipuzkoa san sebastián necesitan y merecen de una intervención decidida por parte del gobierno vasco en materia de infraestructuras no solo

en este caso de otros territorios históricos sino porque ante la incapacidad de gestión también de quienes gobiernan en estos momentos en gipuzkoa y en san sebastián este gobierno vasco los grupos parlamentarios que coincidimos en ese diagnóstico debemos de arrimar el hombro para en la medida de lo posible intentar solucionar o intentar

bueno tal y como ya reconoce el portavoz del partido socialista en lo referente al tramo loiola herrera y más en concreto al viaducto y a la nueva estación se ha redactado un nuevo proyecto que se ha sometido

alegación que ha sido aceptada y que corresponde al ámbito urbanístico del que se ha referido antes el portavoz socialista

a los vecinos del barrio por parte del viceconsejero del gobierno vasco por cierto los vecinos de loiola están muy descontentos por tener el barrio patas arriba

ya que este proyecto no se sometió a disposición pública y tampoco tuvo consignación

patas arriba sin cumplir correctamente el trámite administrativo y financiación suficiente que garantice la ejecución

el veintiuno de diciembre de dos mil nueve se adjudicaron las obras para la construcción del nuevo viaducto entre la estación de loiola y el nuevo puente sobre el río urumea por un importe de dos millónes novecientos noventa y uno mil trescientos veintiséis euros

por qué no se construyeron en ese plazo es muy bonito venir aquí a exigirle al gobierno que culmine las obras a las que se ha comprometido un anterior gobierno

por un importe de algo más de dos millónes de euros y un plazo de ejecución de nueve meses

estado terminado por lo tanto para septiembre del dos mil doce y tampoco se ha terminado nos puede decir tampoco por qué no concluyeron las obras para finales de dos mil doce

en el cuarto punto de la iniciativa se plantea que se formalice el convenio correspondiente para el intercambiador de riberas de loiola guztiz ados